sí gracias presidenta buenos días a todas y a todos hemos debatido esta cuestión en varias ocasiones y
los debates he venido diciendo básicamente las mismas cosas

este es el tercero me he mostrado muy crítico con el contenido de lo que se proponía por resumir modificar una ley ante el hecho cierto de que los que deben cumplirla en este caso los municipios no la han cumplido o no pueden cumplirla

cierto de que bastantes municipios no la han cumplido mientras que otros sí que han podido cumplirla eta

ez dira aipatzen ez dira esaten algo se dice aunque no demasiado

este incumplimiento según la exposición de motivos el gran coste económico que conlleva la redacción de los instrumentos de planeamiento urbanístico y la falta de recursos para costearlos así como la larga duración de los procedimientos de revisión del planeamiento son serios obstáculos a los que han de hacer frente los municipios para poder cumplir el plazo en cuestión es decir se apuntan dos obstáculos para cumplir la ley pero a los que no se pone remedio ni se plantean soluciones de ningún tipo

alargar el plazo e incluir inicialmente la discrecionalidad del consejero eliminado afortunadamente después es decir dos obstáculos por un lado el gran coste económico que conlleva la redacción de los instrumentos de planeamiento urbanístico y por otro lado la falta de recursos

en nuestra opinión habría que resolver estos asuntos en lugar de proponer chapuzas o trampas políticas o jurídicas que

lo que se hapropuesto y lo que se ha terminado aprobando de momento estos asuntos quedan sin resolverse es decir que no sabemos si dentro de siete años tendremos el mismo problema es posible que sí sobre lo que se propone en relación al plazo se propone ampliar el plazo habida cuenta

están a punto de incumplir la legalidad vigente ante este hecho en lugar de ir al fondo de la cuestión lo que el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi proponen es simplemente modificar la ley para ampliar el plazo sin embargo si el asunto de fondo no se resuelve

que muchos ayuntamientos siguen sin adecuar sus planes generales y normas subsidiarias a la ley es decir que muchos municipios siguen sin cumplir

otros muchos no es más fíjense en lo que

original se decía exactamente sin embargo la realidad ha mostrado claramente que las prorrogas en materia de legislación urbanística no siempre han resultado eficaces y han sido incumplidas con frecuencia por lo que resulta necesario completar el régimen estableciendo la posibilidad de que el plazo de la adaptación a la ley en cuestión pueda ser

bien ampliado o bien reducido por orden del consejero o consejera del gobierno vasco competente en materia de urbanismo siempre y cuando las circunstancias así lo requieran la inclusión de esta posibilidad en la ley supone una medida de refuerzo en la seguridad jurídica en la materia esta medida sin embargo se ha suprimido por lo que es razonable pensar que el alargamiento en el plazo

parche en relación a la discrecionalidad del consejero ya opinamos sobre la cuestión y finalmente y afortunadamente se ha eliminado esta posibilidad en conclusión nosotros somos partidarios de exigir a los municipios que cumplan la ley

lo analicemos todos juntos a fondo las razones por las cuales no pueden cumplirla que es justo lo que no se nos ha explicado y esto es lo que queda pendiente por hacer

modificar las leyes porque no se cumplan sobre todo si estas modificaciones legales son simples parches y no se va al fondo de la cuestión que es finalmente lo que se ha

en un país donde prevalecen las chapuzas políticas y las improvisaciones no estamos ante otra chapuza política y otra improvisación

que el plazo para que los municipios adecuen sus planes generales y normas subsidiarias a la ley finaliza ya de hecho ya ha finalizado el pasado día veinte de septiembre a nosotros si que nos parece que esto es una chapuza política y jurídica lo que hay que hacer con las leyes es hacerlas y destacar quiénes cumplen la ley y quiénes no cumplen la ley y si hay que modificar las leyes que se expliquen a fondo las razones por las cuales se modifican las leyes pero que no se nos diga que modificamos una ley por el simple hecho de que hay municipios en este caso de que no las cumplen

una chapuza jurídica y política y por eso no hemos apoyado

propuesta de modificación de la ley del suelo lo que opinábamos de la actual y vigente ley del suelo que lleva ya ocho años

parece que casi todos los grupos están de acuerdo en que hay que modificar esa ley y por lo tanto como ya dijimos en su momento nos parece bien darles

y que no lo hagan porque se modifique la ley del suelo que es de verdad el problema que tiene los ayuntamientos y que tenemos en este país

a evitar la discrecionalidad del consejero a la hora de entrar en vigor o no las obligaciones para los ayuntamientos es el motivo por el cual nosotros

cuanto más tarde en adaptarse a esa mala ley mejor para ellos eskerrik asko damborenea jauna

gracias señora presidenta muy brevemente ya que hemos intervenido varias veces en relación a esta proposición de ley como saben ustedes cincuenta y seis de los municipios vascos han adaptado sus planes generales a la ley del suelo

como ha dicho el señor maneiro que el pasado veinte

inseguridad jurídica aunque ustedes parece ser que no lo quieran ver por lo tanto desde este parlamento teníamos que darle una solución

y el partido socialista para modificarla ampliando el plazo

siempre la autonomía municipal de los ayuntamientos y por eso hemos votado en contra de las enmiendas que ustedes han reservado

las competencias de la gestión urbanística que tienen los ayuntamientos y no vamos a estar de acuerdo

por eso hemos votado en contra de sus propuestas además le vuelvo a decir siempre están diciendo que ayuden a los ayuntamientos bueno que el partido nacionalista vasco y el partido

a estos ayuntamientos incumplidores con esta modificación de la ley cuando es usted el que propone que se les subvencione es decir

la modificación lo han hecho con los ingresos propios de sus ayuntamientos y usted propone que a los ciento treinta y cinco que no lo han hecho se les dé una subvención quién está beneficiando a quién le vuelvo a decir desde el partido socialista estamos de acuerdo con esa propuesta pero donde tiene que estar es en una enmienda presupuestos generales de la comunidad autónoma

de una ley muchas gracias eskerrik asko zaballos jauna

alberga dudas sobre la necesidad y oportunidad de tramitar esta proposición de ley

y normas subsidiarias deberán adaptarse a sus determinaciones en el plazo de ocho años que ha finalizado el día veinte de septiembre pasado

no pueden subrogarse en la postura ni las diputaciones forales ni el gobierno vasco

el plazo siete años más para que los municipios puedan adecuar su planeamiento a las determinaciones de la ley

sin alterar el reparto competencial establecido en la misma entendemos que lo más sensato es ofrecer un nuevo plazo para la adaptación de los planes

no tiene nada que ver con no sé qué intenciones de modificación de la ley del suelo no tiene nada que ver esto es simplemente para evitar esta situación de inseguridad todo lo contrario

lo que queremos es que haya transparencia que la normativa aplicable sea conocida por todos los ciudadanos queremos llevar a la práctica el principio general

queremos que pueda ser materializado el derecho a ser informado de las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada

para respetar las determinaciones urbanísticas y hemos votado en contra de sus enmiendas mantenidas al respecto porque entendemos que las tres tienen algún cierto grado de disparate

en una nos propone una especie de escalera para realizar la adaptación dentro del plazo de quince años con una serie de consecuencias en caso de incumplimiento de estos plazos intermedios y
lamento decirle pero es que usted creo que desconoce la naturaleza jurídica de los planes aldaiturriaga jauna es explicación de voto del partido nacionalista vasco no

con el señor maeztu mesedez barkatu en esta propuesta en la enmienda planteada por bildu que hemos rechazado

es difícil entender señorías que el incumplidor el ayuntamiento que ha iniciado un proceso para

al mismo tiempo que sigue siendo el único que tiene la potestad para proseguir con la tramitación del plan de adaptación nos propone un imposible jurídico desconoce que para materializar la aplicación de la ley es necesario modificar o revisar el plan vigente siempre se necesita un plan señor maeztu

respecto a la segunda su propuesta es que se modifiquen por ley los planes parciales aprobados pero no ejecutados

usted debiera saber que en estos planes se concretan los derechos y deberes de los particulares y cualquier alteración que suponga una merma de los derechos reconocidos

de responsabilidad patrimonial de la administración sobre la tercera

debemos decir que ni este es el lugar ni el momento adecuado para ello recordarle que la competencia

y en su caso si le parece adecuado establecer esta línea de ayudas a otras administraciones debe proponerlo en el seno de los expedientes de la ley de presupuestos generales por todas estas razones señor maeztu hemos rechazado sus enmiendas besterik ez

seré breve no superare los veinte minutos que me corresponden porque hay bastantes cosas que decir y quiero explicar perfectamente las razones por las cuales apoyamos el dictamen

los añadidos que presentamos en su momento y yo quiero empezar recordando que se crea la comisión de investigación de epsilon e hiriko

a la que se unió el partido popular que apoyó además eh bildu que recibió el voto contrario del partido nacionalista vasco y que recibió

la iniciativa la proposición no de ley firmada por upyd y el partido popular aprobada en pleno el veintisiete de febrero de este mismo año

acordar la constitución de una comisión especial de investigación sobre las ayudas las subvenciones y los créditos concedidos por las diferentes administraciones y organismos públicos a las empresas epsilon euskadi e hiriko para

que hubieran podido existir en las decenas de millónes de euros de dinero público echados a perder consecuencia de decisiones equivocadas irresponsables

upyd quería que esta comisión de investigación pudiera realizar tras los trabajos realizados durante todas estas semanas

su propio borrador de informe y a partir de esa fecha los grupos contamos con apenas dos días para realizar las correspondientes alegaciones

upyd realiza finalmente veintitrés alegaciones o aportaciones porque aunque compartíamos globalmente el borrador de informe elaborado por el señor carmelo barrio

de mejora debemos señalar que el tiempo durante el cual se ha desarrollado esta comisión de investigación ha sidoexcesivamente breve parecía que había prisa por acabar los trabajos de esta comisión y que además

y que no todos los grupos han mantenido una actitud lo suficientemente constructiva para poder desarrollar los trabajos de manera óptima el partido nacionalista vasco

y el partido socialista que se abstuvo prefirieron mantener una actitud obstaculizadora más allá de que finalmente el grupo socialista

aunque votara por cierto incomprensiblemente en contra de algunas de nuestras enmiendas y esta actitud obstaculizadora queda reflejada perfectamente en algunos hechos

lo solicitamos en las escasas horas que se habilitaron para presentar alegaciones y en el escaso día y medio que tuvimos para leer las alegaciones o enmiendas del resto de grupos añadimos un dato la última transcripción con testimonios tan importantes como los del señor

llegaron tres horas antes de concluir el plazo para presentar

esta actitud poco colaboradora tuvo su reflejo en las vicisitudes internas del tribunal vasco de cuentas públicas que afectaron a los trabajos de la comisión de investigación

y el grupo socialista al presidente del tribunal vasco de cuentas públicas durante su comparecencia en la comisión al que atacaron por mantener una actitud colaboradora

y simplemente por responder a las preguntas que el resto de grupos le hicimos por cierto estas tensiones internas habidas en el tribunal vasco de cuentas públicas demuestran de paso la urgente necesidad de profesionalizar y despolitizar este órgano luego debatiremos una moción sobre la cuestión no que los consejeros del tribunal vasco de cuentas públicas o algunos de los consejeros del tribunal vasco de cuentas públicas por encima de la labor que cabe exigirles y que tienen

prioritariamente de defender los intereses de los partidos políticos o de los grupos parlamentarios que los eligieron hau pentsatu eta zuzendu behar dugu

dugu respecto al dictamen redactado por el señor carmelo barrio fue en general un buen trabajo lo definimos como suave y moderado excesivamente suave y moderado moderado en este caso

negativamente y quizás por eso contó con el apoyo del grupo socialista y quizás por esto fue redactado de forma suave y moderada para que el grupo socialista

del resto de grupos el dictamen contiene una descripción en nuestra opinión cierta y rigurosa de los hechos ocurridos que desemboca en las correspondientes conclusiones responsabilidades y recomendaciones tanto en lo que se refiere a epsilon como en lo que se refiere a hiriko el dictamen acierta en el relato de los hechos que podemos calificar de riguroso y ajustado a la realidad

responsabilidades y recomendaciones se queda corto de ahí nuestras alegaciones y nuestras aportaciones presidentearen txostena gero batzordearen txostena

en relación a las conclusiones referidas a epsilon nos parece correcto lo que se propone y las conclusiones que aparecen en el dictamen

prácticamente inalcanzables obviando que era muy probable que epsilon no lograra sus objetivos tomando finalmente una decisión claramente equivocada en general

de cesión de rango hipotecario añadimos determinadas alegaciones y propuestas que tratan de mejorar lo que se dice en relación a esta cuestión como que resulta necesario subrayar y destacar que algunas personas de las que tuvieron capacidad de decisión directa en este asunto

de este parlamento y que además están imputados en casos abiertos en los tribunales de justicia y también proponíamos añadir a través de la correspondiente alegación que esta empresa epsilon recibió un trato de favor claro obteniendo por ello fondos públicos de las arcas de la comunidad autónoma vasca que de otro modo no habría recibido además recibió ingentes cantidades de dinero público proveniente del estado consecuencia de la presión política ejercida por un partido político

hacia otro el partido socialista obrero español que gobernaba en minoría y necesitaba aprobar los presupuestos generales ni uno ni otro defendieron con esa actitud el interés general del conjunto de los ciudadanos esto también por lo tanto proponemos que se vote que se vote a favor y que se incorpore a este dictamen y también

del partido nacionalista vasco que pretendía crear en euskadi un polo de innovación relacionado con el automóvil en relación a las responsabilidades

se señala a las personas que formaban parte del consejo vasco de promoción económica nos parece correcto pero señalamos a las personas que formaban parte de ese consejo vasco de promoción económica

señalar expresamente los nombres y los apellidos que formaban parte de ese consejo tanto el partido socialista como el partido nacionalista vasco votaron en contra

miembros de ese consejo vasco de promoción económica volveremos a votarlo después y también se señalan como responsables a las personas que formaban parte del consejo de administración

esas personas esperamos en este caso el voto favorable no sé si del partido nacionalista vasco pero sí al menos del partido socialista está perfectamente justificado que aparezcan los nombres de las personas concretas que formaban parte de esos consejos y también proponemos añadir que el gobierno de españa presidido por josé luis rodríguez zapatero en los años dos mil siete dos mil ocho y dos mil nueve es responsable político

en el marco de unas negociaciones presupuestarias alejadas del contenido estrictamente presupuestario dado que conllevaron la concesión de ayudas y subvenciones a la empresa epsilon

sin existir por parte del ejecutivo central las medidas necesarias de valoración vigilancia y control que pudieran justificarlas estamos de acuerdo por lo demás en relación a las recomendaciones que el dictamen realiza relativas en este caso a epsilon

de hiriko estamos de acuerdo con el relato de los hechos aunque planteamos una serie de añadidos que consideramos interesante que pudieran aparecer

como por ejemplo que resulta sorprendente que una asociación sin ánimo de lucro como afypaida pagara sueldos astronómicos a alguno de sus directivos

sorprendente que unas asociaciones sin ánimo de lucro fueran las promotoras de un proyecto estratégico de primer orden internacional o que resulta asombroso que la práctica totalidad

y que la mayoría de sus gestores promotores propietarios o directivos son o han sido dirigentes o cargos públicos de ese partido también consideramos interesante que esto se incluya en el dictamen y alguna cuestión más que va en esta línea de tratar de mejorar el dictamen

recibieron un trato de favor claro obteniendo por ello fondos públicos de las arcas de la comunidad autónoma vasca que de otro modo

recibió ingentes cantidades de dinero público proveniente del estado consecuencia otra vez de la presión política ejercida por un partido político el partido nacionalista vasco hacia otro

quien gobernaba en minoría y necesitaba aprobar los presupuestos generales y queremos que nuevamente se diga que ni uno ni otro defendieron con esa actitud el interés general

en hiriko proponemos otra vez añadir

del partido nacionalista vasco si unos son responsables en nuestra opinión los otros también lo son y debe aparecer por lo tanto en este dictamen en relación a la recomendaciones que se plantean en el caso hiriko nos parecen todas y añadimos una que dice lo siguiente el parlamento vasco insta al gobierno vasco a introducir las modificaciones normativas necesarias para que pueda hacer un control y un seguimiento de las empresas que reciben ayudas públicas de cualquier tipo y para terminar y en relación a las enmiendas planteadas por otros grupos nosotros seríamos partidarios de poder votar a favor de las tres enmiendas

socialista aunque no aporten digamos demasiado especialmente la última de ellas nos abstendremos en relación a las enmiendas planteadas por eh bildu y en relación a las enmiendas del grupo nacionalistas vascos estaríamos dispuestos a votar pues esas dos o tres enmiendas que plantea el grupo nacionalistas vascos que vienen a tratar de corregir errores gramaticales

votaríamos todas en contra y en conclusión y para terminar votaremos por lo tanto a favor del dictamen aunque sea excesivamente suave y se quede corto no señale la responsabilidades políticas del gobierno de españa y

de las personas responsables por cierto mañana preguntaremos al lehendakari en el caso de que finalmente se apruebe este dictamen qué es lo que va a ocurrir con esas personas

finalmente aprobado preguntaremos mañana al lehendakari en todo caso

la necesidad de controlar los dineros públicos con rigor

que decidan tomar determinadas decisiones asuman su responsabilidad política haya o no haya incumplimiento de la legalidad vigente haya o no haya habido

las haya habido pero en todo caso quien se equivoca pues tiene que asumir su responsabilidad política en este caso y en otros muchos casos una cosa es asumir

y creo que aquí ha habido demasiadas personas responsables políticos que han actuado de manera irresponsable y los paganos de todo esto van a ser otra vez los ciudadanos vascos como en el caso de la multa por las vacaciones fiscales

sobre la que también preguntaremos mañana al lehendakari se toman decisiones equivocadas se toman decisiones irresponsables y los paganos de todas estas decisiones son los ciudadanos no digo que sea fácil gobernar pero quien esté dispuesto a gobernar y quien asuma la obligación de gobernar que hacer es actuar de manera responsable en fin se incluye también y queremos incluir una crítica al modo

esto también me parece interesante señalar cómo se negocian los presupuestos aquí o en el estado a cambio de qué por qué con qué intereses para defender a quién a los ciudadanos o al partido que plantea esas reivindicaciones esto también nos parece un asunto relevante

afecta al conjunto de los partidos políticos tratar de negociar

sin buscar en última instancia la mejora de la vida de los ciudadanos sino otro tipo de cuestiones que en este caso también quedan evidenciadas en ese dictamen y para terminar denunciar otra vez la politización del tribunal vasco de cuentas públicas que en este caso concreto

de manifiesto después debatiremos una moción de upyd al respecto pero creo que es urgente es urgente tomar las medidas legales que sean necesarias entre todos los partidos políticos para profesionalizar y despolitizar el tribunal vasco de cuentas públicas para asegurar que los miembros del tribunal

responden a los intereses de los grupos parlamentarios que los eligieron ahí existe ya se diga lo que se diga una falta de credibilidad manifiesta

cuanto antes en fin ya digo que votaremos a favor del dictamen en todo caso pedimos el voto al resto de grupos para que apoyen nuestras enmiendas

señora presidenta señorías lehendakari y miembros del gobierno bien estamos en el último trámite

especial de investigación en relación con epsilon e hiriko el diez de junio concluyeron esos trabajos se aprobó y se hizo público el dictamen de la citada comisión

a este momento de resolución definitiva los trabajos las conclusiones las responsabilidades las recomendaciones son ya conocidas por esta cámara el dictamen se aprobó con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios a excepción del grupo nacionalistas vascos

todo lo que pudimos observar y estudiar en intensos días de trabajo en comisión para mi grupo ha sido un trabajo fructífero

hemos conocido más a fondo determinadas formas de actuar en el seno de la administración y nos sirve fundamentalmente para una cuestión para buscar

al futuro de determinados comportamientos y de determinadas decisiones incorrectas el grupo parlamentario popular por razones obvias comparte

el dictamen en relación con los trabajos de la comisión de investigación de las ayudas públicas a los proyectos epsilon euskadi e hiriko es un documento político que ha tratado de buscar la objetividad y el análisis de dos fenómenos empresariales con unas especiales características de falta de fundamento

y jurídico y de valorar el hecho de que hay algo muy importante que algo muy importante ha fallado en la estructura pública en relación con unas decisiones de apoyar apuestas empresariales al margen de unas condiciones básicas previas para este tipo de proyectos

con el texto del dictamen no quiere más que constatar que se ha tratado de efectuar un análisis de lo sucedido con estos dos proyectos empresariales vinculados a la automoción

y la documentación parlamentaria y el resto de información y documentación oficial se pueden obtener una serie de conclusiones claras sobre lo que constituyeron sendos fracasos empresariales sustentados en dinero público casi exclusivamente

en el ámbito de actuación que nos compete formas de actuación y responsabilidades públicas que han favorecido en el inicio de los proyectos o en el transcurso de los mismos

o al margen de procedimientos y reglas es una cuestión obligada para los trabajos de la comisión es una cuestión obligada para los trabajos de este parlamento

sobre todo para que estas experiencias improductivas y desalentadoras así como desequilibradas y al margen de la igualdad de oportunidades no se vuelvan a producir no se busca otra cosa que cumplir con el deber de control parlamentario de la acción de los gobiernos

y programas económicos de fondos públicos puedan tener en relación con su incorrecta aplicación

parlamentarios analizamos políticamente las consecuencias de la acción de los gobiernos no somos jueces no somos fiscales ni la policía no dictamos

pero sí queremos saber queremos conocer los procesos de decisión y queremos cumplir con el deber para el que la ciudadanía nos ha colocado en estos escaños controlar su dinero y estudiar fórmulas

no se vuelvan a producir es un documento político pero sustentado en datos técnicos y objetivos que hemos podido comprobar

han analizado estos fracasos empresariales fundamentados en dinero público no es un trabajo fácil es un espacio temporal tenso y comprometido y corto a todos nos debe mover la verdad y el concepto más cercano a la objetividad nadie lo pasa bien en esta responsabilidad les aseguro que menos el que tiene que construir un documento de análisis y de valoración

pero con lo que dios nos da a cada uno se hace lo que se puede con dedicación y con responsabilidad profesional señorías los proyectos

no nos han dado la mejor imagen de nuestras capacidades económicas industriales y de emprendimiento han sido proyectos fallidos

han sido sustentados en decisiones políticas de órganos políticos y políticamente los estamos analizando y han tenido repercusiones al margen de la política

judiciales laborales y jurídicas que todos hemos podido apreciar y conocer claro que a los ciudadanos nos gusta nos entusiasma incluso la fórmula uno claro que a todos nos gusta un futuro de coches y vehículo no contaminantes y ecológicos pero

lo que no nos gusta de verdad es que nos tomen el pelo no nos gusta

se revistan y se disfracen proyectos e ideas sin garantías sin solvencia de necesidades estratégicas y de apriorísticos éxitos empresariales que ni siquiera se han podido explicar con fórmulas de mediana viabilidad

y con proyectos comerciales anclados en la realidad

supuestamente nos iba a conocer por la fórmula uno de epsilon euskadi en los circuitos que vemos por la televisión o por el coche eléctrico que iba a recorrer no sé qué ciudades del mundo esperemos que ahora por lo menos sepa que cuando algo falla en el motor del proyecto de nuestra economía

se analiza y se trata de arreglar esa sí que es nuestra responsabilidad les aseguro que a este parlamentario le encanta comprobar los éxitos de nuestras empresas pero también les digo que el principal activo de los vascos y nuestra seña de identidad y referencia además de nuestra capacidad de trabajo es nuestra seriedad y el emprendimiento

nuestra obligación es garantizar la transparencia y el rigor en los procesos de decisión política que benefician a unos por encima de otros en los procesos de adjudicación económica que eligen beneficiario y que optan por favorecer a unos en concreto en determinadas adjudicaciones económicas si hay que apoyar

hay que hacerlo con un previo conocimiento del parlamento de las instituciones hay que explicarlos a priori no tratar de justificarlos a posteriori hay que actuar

con otras apuestas industriales tecnológicas o desarrollo empresarial

al margen de la realidad con voluntarismo institucional

de un sustento económico y estratégico empresarial básico alguien ha mezclado desde luego por ser suaves deseos con necesidades y las instituciones

pasado veintisiete de febrero la creación de esa comisión de investigación y hoy después de sus más de diez sesiones de la comisión y muchas horas en comisión y muchas horas fuera de la comisión

tenemos que recordar también han hablado que era necesario estudiar este tipo de proyectos podemos referir en concreto a las juntas generales de álava que lo hicieron en

unánime en relación con epsilon en ese sentido estamos trabajando

y una vez sabida las irregularidades los problemas el funcionamiento de epsilon en euskadi pues hablaron de que en el caso de que se detectase cualquier tipo de irregularidad se solicitaba que se aclaren se depuren las responsabilidades de los involucrados tanto a nivel político económico como judicial buenos ya sabemos que la andadura judicial

en relación con sentencias claras pero la andadura política la estamos y la hemos trasladado en este parlamento

sino también por el deseo y el acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios en otras cámaras que se han visto también afectadas por estos fracasos empresariales con dinero público

siendo ellas habiendo aportado fondos claramente a este desarrollo empresarial en relación con

las conclusiones son claras el consejo de promoción económica declaró en dos mil siete a epsilon euskadi como proyecto estratégico

sin sólidos fundamentos industriales comerciales y de generación de mantenimiento de empleo solamente expectativas

sabiendo que existía un riesgo alto de que epsilon no logrará sus objetivos es responsable de una decisión el fundamento y el soporte de análisis empresarial necesario

constituía un proyecto empresarial con una ínfima aportación privada de sus promotores y propietarios cuando comienza a disminuir la inyección de dinero público el proyecto epsilon euskadi comienza a flaquear estrepitosamente epsilon euskadi obtenía muy pocos ingresos que no

y tenía un elevado endeudamiento el diseño de la operación de cesión de rango hipotecaria y compromiso

de la gestión de riesgos ofrecía un resultado perjudicial para el parque tecnológico de álava en cualquier caso si el proyecto funcionaba porque los ingresos eran principalmente públicos sus promotores se hacía con una empresa que al menos estaba tasada en más de veintidós millónes de euros

el noventa por ciento de la empresa si el proyecto fracasaba el parque tecnológico de álava debía de adquirir la deuda con las entidades financieras algo desproporcionado

la rotundidad de los informes públicos y privados con los

que se debieron evitar por parte del consejo de administración del parque tecnológico de álava con otro tipo de actuaciones acordes con la legalidad nunca se habían realizado en la red de parques tecnológicos de euskadi operaciones de cesión de rango hipotecario y de compromiso

como lo ratifica la documentación del gobierno nunca se había realizado tal operación de tanto riesgo asimismo la sentencia del juzgado número uno de lo mercantil

y culpable en relación con la gestión de una empresa anclada en fondos y ayudas públicas desde el inicio el gobierno vasco en la anterior legislatura el gobierno socialista y otras administraciones públicas tuvieron a partir de las operaciones de dos mil nueve que buscar fórmulas para amortiguar el impacto a las arcas públicas de los problemas surgidos

empresarial se ha tenido que acometer un proceso complejo de información

los efectos de la mala gestión y de las decisiones adoptadas que pretendían favorecer a epsilon euskadi

como constata y como se describe en el informe la administración general del estado aportó subvenciones públicas

con apuestas que venía avaladas por el parque tecnológico de álava

se habla de las responsabilidades en relación con epsilon a la vista de lo referido está bien claro que se constata que las personas que formaban parte del consejo vasco de promoción económica en su sesión número once de veintiocho de noviembre de dos mil siete

y propusieron al consejo de gobierno la concesión de una subvención de fondos estratégicos ahí está la responsabilidad política y también las personas que formaban parte del consejo de administración de la sociedad parque tecnológico de álava sl en su decisión de dieciséis de marzo de dos mil nueve y en relación con las operaciones de cesión de rango hipotecario

hipotecarias manifestaron su conformidad con las referidas operaciones actuaciones que llevaron a esa operación de riesgo que todos conocemos y que se describe también en el dictamen de la comisión de investigación recomendaciones

muy importante yo creo que es un trabajo que tendremos que tener en seguimiento en este parlamento en relación con lo que tenga que ser el trabajo a seguir a la vista dela necesidad de un mayor control por parte de las aportaciones públicas

es importante realizar una serie de recomendaciones que el parlamento vasco por ejemplo

un informe de fiscalización de las ayudas subvenciones y partidas presupuestarias prestamos avales convenios y contratos otorgados a la empresa epsilon euskadi sl y a la asociación de

también instar al gobierno vasco para que realice las reformas y adaptaciones necesarias para reforzar con procedimientos de mejora

y su función de estudio y evaluación de las propuestas dentro de los programas de ayudas

y reforme la normativa reguladora de la actividad y objeto social de la red de parques tecnológicos de euskadi con el fin de que se garanticen procedimientos

a un profundo análisis y actualización de las funciones atribuidas a los miembros de los consejos de administración de la red de parques tecnológicos también el parlamento vasco insta al grupo spri a que clarifique y reforme en aras a la legalidad y a la transparencia de seguridad jurídica lo relativo a los contratos

en situaciones contrarias a los requisitos que establece la jurisprudencia en relación con las ayudas de estado

de estudio y aprobación de los distintos informes de la spri o de la dirección de industria del gobierno vasco antes de realizar las correspondientes propuestas

como la que se analiza en el presente dictamen parlamentario son recomendaciones importantes en este caso en relación con

de que se avance en esos aspectos de clarificación y de conocimiento de esas cuestiones en relación con

con el asunto del coche eléctrico tenemos que decir también

incuestionable se ha financiado prácticamente en su totalidad con ayudas públicas del gobierno central también del gobierno vasco así como en menor cuantía de la diputación foral de álava

de acabar bien perdidas definitivamente o bien

sin haber apenas invertido en su realización adquisición y utilización las relaciones económicas entre asociaciones el instituto tecnológico de massachusetts el círculo norte las empresas consorciadas y subcontratadas suponen un complicadísimo enjambre de operaciones

analizar valorar y clarificar el gobierno vasco careció de una falta de visión estratégica al no haber apreciado los riesgos en relación

responsabilidades en este caso está bien claro que sería necesario y es necesario y por eso también las recomendaciones en aras al rigor y a la información especializada y definitiva disponer de informes oficiales de fiscalización de determinadas ayudas

y décimos en relación con las responsabilidades que la dirección de la spri que gestionaba los programas etorgai y ekintzaile

con un proyecto que se materializa en euskadi con fondos públicos y un deber de exigencia de auténticos planes de viabilidad y empresariales

y en consonancia con los planes iniciales también como nos referíamos a la cuestión epsilon en relación con la cuestión hiriko hay recomendaciones que yo creo que tienen que ser también de referencia para

a la cámara y al gobierno en relación con futuras actuaciones en primer lugar volvemos a recordar que el parlamento vasco inste al tribunal de cuentas del estado a que realice sabemos la financiación que recibe del ministerio este proyecto a que realice un informe de fiscalización desde las distintas ayudas subvenciones avales prestamos contratos y convenios

las asociaciones afypaida y denokin así como al resto de empresas relacionadas con el citado proyecto que esas empresas

han recibido ese dinero público del conjunto de las administraciones públicas también instamos en este caso al tribunal vasco de cuentas públicas a que realice en el ámbito de sus competencias y con carácter de urgencia un informe de fiscalización de las ayudas subvenciones prestamos contratos convenios o cualquier otra fórmula de apoyo económico

así como las empresas relacionadas con el proyecto hiriko que han recibido aportaciones aquí nuestras de nuestras instituciones procesos económicas provenientes de fondos públicos de la comunidad o

es importante que el parlamento vasco inste al gobierno clarifique a que regule también como nos referíamos antes en aras a la eficacia a la transparencia y a la seguridad jurídica lo relativo al uso y control de los fondos públicos que se destinen a asociaciones sin ánimo de lucro y también como cuestión importante

formalice la petición de devolución de las ayudas y subvenciones

a afypaida son conclusiones responsabilidades recomendaciones

fruto de un trabajo parlamentario de análisis estas han sido

esperemos que podamos seguir trabajando sobre bases que son buenas las de los trabajos de esta comisión de investigación para que no volvamos a tener en euskadi

hirikos fracasos empresariales con dinero público muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den reyes jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi hoy aprobaremos definitivamente las conclusiones de la comisión de investigación sobre hiriko y epsilon y lo primero que quiero resaltar es que me parece muy importante que el parlamento

las irregularidades o las ineficiencias o cualquier tipo de prejuicio

reitero hoy que los socialistas seremos intransigentes con cualquier forma de corrupción o de falta de transparencia de las administraciones públicas provengan

la actuación del grupo socialista ha sido y es coherente con esta afirmación

será porque el gobierno socialista lo puso en su día en manos de los jueces y si se determinan responsabilidades políticas es fundamentalmente por dos razones

y porque nuestro voto ha sido determinante para llegar a las conclusiones que hoy apoyamos beraz ondorio judizialak badaude

es que este impulso se ha concretado en varias actuaciones en que la pasada legislatura mi grupo impulsó aclaraciones en el parlamento en dos mil once

y fue el gobierno socialista el que puso en manos de la fiscalía un informe

porque pensábamos y el tiempo nos ha dado la razón que era una forma de ayudas que no debían hacerse

de la operación es porque nosotros nuestro gobierno el socialista lo llevó allí

y una muestra de lo que no debe hacer un gobierno responsable porque seguimos sin saber qué motivo llevaron al parque tecnológico de álava

que epsilon tenía con él y pasar esa prioridad a las cajas vital

ceda la protección del dinero público después el gobierno socialista compró ese prestamo

que si se ejecutaba a lo que obligaba lo que habían firmado los anteriores responsables

seis millónes de euros y ya en esta legislatura el grupo socialista ha solicitado las comparecencias

gobernaban el departamento así como la de la actual consejera de desarrollo económico de que explicaran sus actuaciones para ello pedimos incluso habilitar el mes de enero como así se hizo así que hoy debatimos un dictamen cuyas conclusiones muestran lo ocurrido

porque unos empresarios privados han gestionado mal el dinero público porque en el gobierno vasco en una época de bonanza económica

más desde el voluntarismo de construir un proyecto automovilístico que a partir de un análisis de riesgo riguroso lo que sin duda supuso una mala gestión

en su integridad porque entendemos que recoge los aspectos clave que se han planteado en los trabajos de la comisión por una parte se establecen con nitidez los errores cometidos con epsilon un proyecto empresarial sin base sólida

porque solo el dinero de la administración y no el ínfimo capital privado para algo tan ambicioso hizo posible que ese proyecto fuese engordando hasta que estalló el dictamen también es claro al señalar que la cesión de rango hipotecario a la que me he referido

fue una operación absolutamente inédita sin base legal que ha provocado un perjuicio añadido a las arcas públicas y finalmente queda claro que hubo responsabilidades políticas

eran miembros de un consejo por designación política no técnica como eran de designación política los miembros del consejo de administración del parque de miñano que avalaron con su mayoría con dinero de todos los vascos los créditos pedidos por la administración único de epsilon

por concluir pero sustancial de este proyecto también está en el documento que aprobamos

a proyectos de desarrollo tecnológico mediante los procedimientos establecidos

pero por el contrario que esos recursos fueron mal gestionados por la empresa que los recibió y no solo mal gestionados

el dictamen es necesario analizar valorar y calificar el complicado enjambre de operaciones que las empresas consorciadas y subcontratadas

afortunadamente quien tiene los medios para indagar adecuadamente la fiscalía ya lo está haciendo creo que es el ámbito

continúen ahora fuera ya de este parlamento aquí hay que preguntarse qué impulsó a unas personas sin experiencia ni conocimientos en el sector del automóvil

en el que no participaron además las empresas del sector de automovilístico vasco

y alguna que se acercó dejó el consorcio rápidamente por la mala gestión que se llevaba porque se pagaban sueldos elevadísimos y se pagaron trabajos

los graves problemas de homologación del prototipo eso entre otros problemas que han aparecido

en definitiva se dilapidó el dinero público y podemos decir que hiriko es el ejemplo de lo que no debe ser un proyecto empresarial

en el que se quiere desarrollar sin valorar adecuadamente problemas de desarrollo tecnológico y sobre todo sostener únicamente con financiación pública lo que no es

llevado con una pésima gestión y con final en una sentencia judicial de concurso culpable

aquí y tratando de sacar enseñanzas para que no vuelva a ocurrir por eso el grupo socialista ha presentado tres aportaciones

ampliar o aclarar su contenido la primera aportación pretende que el gobierno vasco adopte las medidas necesarias para que las patentes

para los desarrollos tecnológicos del proyecto hiriko se conserven como un activo de esa empresa así se impediría que las patentes pudieran pasar a manos privadas

con el que la empresa puede devolver lo que la administración le reclame lamentablemente el gobierno no ha actuado según la consejera porque no hacía falta porque esas patentes

al haber sido superadas por otras en realidad entendemos que la consejera está disimulando su falta de interés por intervenir porque valgan más o menos lo que habría que ver

si valen más o menos esas patentes siguen siendo un patrimonio que no hay que ceder

el que pide la documentación recibida por este parlamento porque ve indicios de que el asunto de las patentes pueda constituir un delito de alzamiento de bienes y esto

con la segunda aportación que presentamos queremos ampliar el control de los fondos públicos porque el dictamen

a las asociaciones sin ánimo de lucro y nosotros proponemos ampliarlo de forma que el parlamento vasco mejore el actual sistema de concesión de ayudas también en el ámbito industrial especialmente en lo relativos a las ayudas y subvenciones

es una aclaración técnica respecto a hiriko que entendemos necesaria porque en el dictamen se atribuye

in vigilando en relación a las ayudas concedidas para desarrollos tecnológicos al amparo de los programas etorgai y ekintzaile pero resulta y es un añadido una aclaración que esos dos programas no se corresponden exactamente con lo que dice el dictamen con el programa etorgai se conceden ayudas para financiar proyectos industriales

no actividades empresariales además el ex consejero de industria señor unda ha explicado en este parlamento no se le aplicó ningún tratamiento favorable hasta el punto de que aunque la evaluación técnica para el programa etorgai

no se le otorgó por tres años como es habitual sino que se le dio año a año

cuya cuantía siempre se redujo se ajustó respecto a lo solicitado hubo por lo tanto un seguimiento estricto con medidas cautelares

sobre la marcha del proyecto empresarial pero los desarrollos tecnológicos

no para un proyecto empresarial repito superaron la evaluación correspondiente y por tanto recibieron las ayudas que según la normativa les correspondía

ahora bien está claro dicho esto que el sistema de concesión e ayudas debe mejorarse y por eso en algunas sesiones de este parlamento se le ha pedido a la consejera de desarrollo económico y hoy lo proponemos aquí en nuestra segunda aportación

es un programa de apoyo a emprendedores que tiene por tanto la vocación de apoyar nuevas ideas empresariales aunque algunas de ellas luego no salgan adelante por eso las ayudas son modestas un máximo de treinta mil

y antes de acabar quiero aclarar que en la comisión de investigación votamos en contra de todas las alegaciones de los distintos grupos porque este dictamen recoge claramente lo que ha ocurrido y lo consideramos correcto la mayoría de los grupos sobre todo

porque ha tenido esta comisión un tránsito tortuoso por interés de algunos grupos políticos de utilizarla

públicamente para obtener una relevancia política que más o antes que para buscar fundamentalmente la verdad de lo ocurrido así que entrar en modificaciones solo serviría para desvirtuar lo que para nosotros

que es lo siguiente por un lado se hace un diagnóstico sobre las razones que han llevado a perder entre los dos proyectos cerca de sesenta millónes públicos se visualiza también que las personas que accedieron a las subvenciones se valieron de relaciones personales y de un impulso más de voluntad política que empresarial para obtener las ayudas públicas se determina dónde se produjeron los errores tanto en la concesión de ayudas

o quienes no fueron diligentes en la vigilancia eran responsables políticos

para que estos fiascos no vuelvan a producirse para que no se vuelvan a apoyar proyectos privados

para recuperar los fondos públicos que se hayan gestionado mal por eso votaremos en contra de todas las alegaciones para preservar en su integridad el dictamen

deben servir para afianzar la idea de que los proyectos en los que se invierte dinero público deben guiarse por el análisis riguroso de su viabilidad y por el gasto

aún en épocas de abundancia presupuestaria y por supuesto los proyectos en los que se invierte dinero público tienen que tener visión de país pero no ser visionarios porque la obsesión por crear símbolos que identifiquen la grandeza de un país suele conducir a desastres como en este caso en el que la pretensión de que euskadi apareciera como una potencia

y un coche eléctrico condujo el despilfarro del dinero público por eso yo creo que la pregunta que debieran haberse hecho los responsables del gobierno vasco en su momento es

lo que es de todos porque la respuesta a esta pregunta se contiene probablemente la base del código de actuación de un buen responsable público y para no eludir finalmente un emplazamiento que ha hecho el señor maneiro respecto

quiero decir que como apunté en la comisión que las subvenciones que han venido del gobierno de madrid

del coche eléctrico específicamente se hicieron en el marco

como hay en todos los gobiernos del mundo legítima en la cual los grupos aportan sus ideas o

para enriquecer el presupuesto eso es legítimo y normal en el desarrollo de colaboración de grupos en la elaboración de los presupuestos

en el caso de epsilon se dieron las ayudas en un momento

en toda españa dedicaba o el gobierno de la nación dedicaba miles de millónes a ese desarrollo ayudas de ese tipo en toda españa lo que se conoció como el parquetazo que fue un impulso a

en todo el estado y en el caso de hiriko era

apuntaban al desarrollo del coche eléctrico es decir era el que correspondía a las ayudas que se solicitaban lo que entendemos que no se hizo bien y creemos que es así es que esos proyectos aún

en las ayudas que se daban en el momento como programa político de desarrollo

parece que no fueron analizados con la diligencia y la profundidad que se debería y esa responsabilidad política que

la han sancionado las urnas y nosotros entendemos que eso no debe hacerse así

en cualquier caso para el análisis de este asunto consideramos que lo lógico es

las preguntas en el congreso de los diputados
pero estamos dispuestos a ver cualquier cosa muchas gracias eskerrik asko reyes jauna

zein izan den azalduz para empezar por el principio hay que dejar claro que epsilon e hiriko

de ninguna de las maneras por una razón muy simple nunca fueron un proyecto empresarial epsilon e hiriko simplemente fueron dos proyectos económicos vacíos de contenido

único de optar a millónes de euros públicos ese era el único objetivo que se perseguía y así actuaron los responsables de dichos proyectos desde el inicio

innovadores fracasados ya que ambos se acercan más a un despropósito que a un fracaso

un proyecto fracasado es fabricar un cohete para mandarlo a marte y que explote en el camino lo que epsilon e hiriko fueron

que aspira a llegar a marte y claro esa bicicleta voladora no solo no llegó a marte sino que tampoco llegó ni tan siquiera a tener unos pedales lo que sí llegó a su destino fue el dinero que es el dinero que llegó al destino de los empresarios cercanos al pnv hasiera hasieratik proiektua bideragarritasun txostenik gabe

ateratzeko aukerarik nola lortu zituen bada horrelako diru laguntzak cómo consiguieron semejantes subvenciones entonces muy sencillo

avalados no por el contenido de los proyectos ya que los objetivos se modificaron durante las subvenciones y eso no hizo variar las subvenciones ni tan siquiera se revisaron dichas subvenciones una vez que los objetivos se habían cambiado

sino el quién y el quién en esta historia está claro el quién

el pnv a través de las personas cercanas a su partido y muy bien relacionadas desde siempre con las administraciones públicas se hizo con dos proyectos fraudulentos pero que tenían una cosa en común la facilidad de optar a dinero público de manera directa y rápida hablamos de élites extractoras de dinero público

ezberdinduko ditut debemos recordar como antecedente que todo surge en un momento concreto en el que el automovilismo se convierte en un foco de atención mediática sobre todo en el automovilismo en el área de la competitividad deportiva

en ese momento epsilon ya contaba con toda la ayuda pública posible ya que tal y como se denunció por el tribunal vasco de cuentas tenían un alquiler por debajo del precio del mercado directamente fijado sin ningún criterio

duen lur eremu batean esta tal y como reconoció el propio villadelprat es una de las razones fundamentales por la que epsilon se decide finalmente por optar a fijar su sede en el parque tecnológico de miñano ahora empieza a desvelarse nombres que en tanto epsilon como el hiriko coinciden

echave persona relacionada históricamente con el partido nacionalista vasco consejero nombrado por este partido en la vital

hay que recordar que cuenta con negocios que van desde las canteras hasta los concesionarios algún día habrá que hablar también de las concesiones que se hicieron para las canteras y de las explotaciones de las mismas y en qué manos están echave

en esta empresa también estaban personas que posteriormente entran a formar parte del proyecto hiriko estos son un socio de echave en la empresa de productos asfálticos de atauri y los otros son constructores y promotores así vemos que los promotores de la empresa circuito del norte

a las muy nobles artes en las que han existido y existen los mayores índices de evasión blanqueo de dinero sobrecostes en las adjudicaciones

de nuevo su oportunidad en la aparición del proyecto hiriko entrando como socios hain justu

y es que debemos recordar cómo se hacían las cosas por aquel entonces en miñano y en ese momento

en el caso de miguel están involucrados altos cargos del partido nacionalista vasco

malversación de fondos públicos falsedad documental en documentos públicos privados o mercantiles y alteración de precios en concursos y subastas públicas

continúo hablando de las personas que impulsaron los proyectos en el caso de hiriko hay dos asociaciones sin ánimo de lucro que se esconden bajo este título

los tejemanejes de sus directores por un lado está afypaida asociación promovida y gestionada por jesús echave por otro lado se encuentra denokin

y que luego dilapidó son los máximos responsables del fraude de hiriko

entre los fundadores de dicha sociedad para la promoción de proyectos innovadores

se encuentra el ex alcalde de mundaka unai rementeria entre otros

en trápaga persona muy conocida en bizkaia por las labores que realiza para el partido

no realiza su actividad directamente bajo el objeto social que ostenta y por otro lado que tras destaparse el fraude de hiriko ha pasado a ser una empresa privada

que conformaron dicha empresa o dicha asociación ahora han pasado a ser activos privados en manos de las personas que siguen en la gestión de la misma entre ellos el señor macías otro pelotazo denokin contrató para este proyecto a dos personas carlos fernández isoird

y que el proyecto de desarrollo del coche hiriko pudiese traerse aquí todo ello costó de inicio varios millónes de euros

del proyecto y urkidi el que realizaba las relaciones comerciales posteriormente aparecerán tras el fracaso del proyecto hiriko y la aparición del proyecto tokiko junto a las empresas

y que costó millónes de euros a las arcas públicas así hemos podido comprobar que entre los impulsores las conexiones están claras otra pregunta a responder es existen responsabilidades políticas sin duda que existen

responsabilidades aparecen con claridad la primera de todas proviene del acceso mismo que tienen estas personas

al dinero de las arcas públicas para poder financiar proyectos que en ningún caso contaron con financiación externa ni privada esto no puede hacerlo el común de la ciudadanía

recordemos también como el proyecto de epsilon se definió como estratégico por el gobierno de ibarretxe un proyecto que se basaba en el área de la promoción

pero que en ningún caso realizó ninguna de esas tres tareas con dinero propio con dinero salido de sus bolsillos sino que todo se realizó con dinero público recordemos también

si bien lo que habría que decir a la ciudadanía es que tal como reconoció el señor alberto fernández responsable de realizar las evaluaciones de las spri el señor

que es cada persona de su equipo realizaba un análisis evaluación y realización de informes para su aprobación de por lo menos dos proyectos de esa envergadura al día proyecto cuyas memorias son

analizan y auditan en un solo día y no solo eso sino a pares por una sola persona

que la de que los proyectos que cuentan con un empujón político son los que se cuelan por los filtros de la evaluación pública posteriormente

un aval fraudulento fuera de la normalidad y sin caso precedente como es el aval por dieciséis millónes de euros

avalando un prestamo que tenía con dos entidades que ahora conforman kutxabank

habrá que decir que este año por lo menos se ha ampliado el capital a aportar en el centro de empresas e innovación de álava por las pérdidas que se arrastran casualmente desde el mismo año

a nivel del gobierno vasco pues evidentemente la persona que tenía la máxima responsabilidad política la persona que ha hecho de un problema privado un problema público que ahora alguien debe revertir ana aguirre porque seamos serios hoy la sociedad de araba no necesita ni un pabellón preparado para la

que no se utiliza ni se puede encontrar ninguna utilidad para el mismo

y ya vamos dando varios nombres que se suman a los que se señalan en el dictamen original en el caso de hiriko y tal y como hemos venido diciendo

dar las subvenciones y además aquellas personas que cuando los objetivos del proyecto variaron como fue en el caso hiriko mantuvieron las ayudas eso no es aceptable

adibide bat esas ayudas fueron concedidas como base para aprobar los presupuestos del partido socialista obrero español esas ayudas defendían el interés particular

no es casualidad la vehemencia con la que el partido nacionalista vasco defiende en madrid los intereses empresariales vascos mientras acepta de buen gusto los recortes

algún día y quizá en un día no muy lejano alguien mirará los conceptos por los que se han obtenido las subvenciones directas de madrid para proyectos empresariales muy concretos y quizá podamos ir viendo cómo los beneficiarios de dichas subvenciones

muchos de los objetos subvencionables no se acaban por cumplir aviso que en poco tiempo hablaremos de ello en este parlamento también gauzak horrela uda aurreko

pero de esa investigación nada vale nada pero ojo

son aquellos mismos que tienen patentes similares a las de afypaida y estas nuevas patentes superan a los de los procesos de investigación al cien por ciento con dinero público

mientras que afypaida no la señora arantza tapia nos dijo que las patentes de afypaida no valían nada porque ya habían sido superadas por otras que desarrollan empresas vascas el problema

es que sabe que miente porque no es lo mismo que esos desarrolladores produzcan un hiriko o algo muy similar como dijo el señor

por poner un ejemplo ya que ni la producción sería vasca

salvo en los bolsillos de los empresarios en algo sí que le voy a dar la razón a la señora tapia y es que han sido superadas pero no técnicamente

caradura y falta de respeto por el dinero público que tienen aquellas empresas que se han hecho cargo del nuevo proyecto gure iritziz

arduradun politiko gisa el nombre de arantza tapia es otro nombre que debería aparecer como responsable según nuestra opinión

ikustea y ahí es de reseñar y de agradecer seguramente por parte

la postura que mantuvo el partido socialista de euskadi durante toda la comisión vergonzante sobre todo al no dejar a las personas que

obtener información en esa comisión de investigación recibir la información y recibir

aquellas personas involucradas en este caso ustedes paralizaron conjuntamente con el partido nacionalista vasco que eso fuese posible ustedes son responsables de que

ustedes no han aportado absolutamente nada a esta comisión sino todo lo contrario ustedes han sido una piedra más para descubrir la verdad no

ustedes no han participado ustedes no han velado por la verdad y porque la verdad surgiese comisión de investigación y es que hoy la cuestión no es cómo resolver el dictamen ya que este está amputado por la falta de información desde un inicio sino es cuestión de dar cuentas ante la ciudadanía de dos fraudes empresariales subvencionados con dinero público y que posiblemente no tengan ningún tipo de consecuencias políticas

todo cuanto antes si esa es la idea de alguno o alguna aquí le diré que no puede andar más equivocado nada acaba hoy hoy es el principio de muchas más peticiones de aclaraciones peticiones de respuesta y de una investigación que desde eh bildu

clientelares que parasitan nuestras instituciones y sacan el dinero público para repartírselo habrá más epsilon e hiriko en el futuro eso lo podemos asegurar

porque todos aquellos empresarios y personas cercanas al poder que han vivido del dinero público necesitan seguir recibiendo dinero su problema es que hoy hay menos para dar por lo que vemos claramente como aquellos que antes no comían en el mismo pesebre ahora se ven obligados a hacerlo y por ello aparecen nombres relacionados en proyectos económicos diferentes

ahora solo conocemos como decía la punta del iceberg de la corrupción vasca y esas memorias

de verdades comprobables de la manera en que creo se debe hacer política el servicio un país y sus ciudadanos

inocente de mí creí venir aquí puede que se hayan hecho las cosas mal y yo

es la manipulación y perversión de datos de documentos y de frases elegidas a vuela pluma con intención de hacer daño al opositor convirtiéndole en contrario

aunque a alguno le pueda perjudicar no parezca suficiente porque el daño provocado parece escasamente gravoso cuando se buscan intereses como los electorales que son sanos pero que son espurios cuando se buscan de manera exclusiva sin el complemento

y digo todo esto como introito a lo que verdaderamente nos concita

y que tal cual se aprobó en la comisión con nuestro único voto en contra

pero de verdades parciales verdades más tramposas que la pura mentira

eran verdades partidas lanzadas para engañar conscientemente al lector o escuchador de las mismas eran verdades parciales que dirigían hacia conclusiones tramposas hiperbólicamente engañadoras para intentar generar una sensación

cuando todos aunque los comisionados teatralicen sus gestos

que si bien se pudo hacer mejor desde la administración pública mal no se hizo la falacia

insisto concursales en concurrencia con los demás en igualdad de oportunidades y valorados por técnicos objetivos y expertos

pues muy sencillo por ocultar al lector una circunstancia que daría a las subvenciones un valor de verdad de sinceridad y si además están dadas concursalmente por diferentes administraciones más grado de veracidad

políticas de dañar como manera de intentar vencer respecto a la archiconocida operación del parque tecnológico en epsilon y el cambio de rango de crédito se llegan a citar nombres concretos de personas en la operación del dos mil nueve

parece ejecutado por un espectro sin que ninguna persona participe y ahí radica otra argucia de las de peor calaña que se pueda leer en el documento

interesa citar a alguien del dos mil nueve más si es un hombre vinculado a otros asuntos

puede ofender a quien se necesita para apoyar el informe eso sí todos los nombres que van saliendo y que tienen su vida privada y laboral

y si de lo que esta comisión pueda dirimir con medias y verdades se coligen consecuencias en esos ámbitos nada importará

qué nos importará cuando asuntos de esas personas queden sobreseídos ya ni nos acordaremos de ellos ni de epsilon ni de hiriko

y nosotros seguiremos haciendo política de un modo bastardo el señor unda y su equipo en su informe sobre lo sucedido por el parque tecnológico

que fue el propio asesor jurídico quien remitió el formato de contrato que finalmente se suscribió la comisión no obstante lo solicitó se le remitió

y a la hora de aprobarlo el resto de la comisión votó y hoy votará

no existe así se construye el relato así se construye una verdad puede una mayoría ocultar una objetiva verdad esta comisión lo ha hecho

que quien decidió aquel contrato de cambio de rango fue el asesor jurídico del parque y transferimos la responsabilidad al consejo de administración del parque otra verdad bastarda otra falta de transparencia con la ciudadanía se nos llenará la boca de transparencia

distan mucho de las teorías se ha pervertido la verdad constatable en la documentación una vez más buscando apoyos nunca tras un relato fiel la narración de lo realizado en el dos mil doce del parque tecnológico se describe con puntillosa perfección calcando palabras del consejero en la comisión sin que obre un solo papel en la documentación que lo demuestre pero vale para decirle al pse que ellos sí valen no estos ladrones del pnv

porque el fin es acabar con su valor de buenos gestores los medios pues da lo mismo el fin justifica cualquiera de ellos se ha llegado en este informe a la sutileza de la perversión

como que parezca inocente la expresión de sic informe de la oficina de control económico cuando realmente es un informe del director de tal oficina las oficinas son neutras los directores son cargos públicos y por tanto subjetivos

el mayor el superior el campeón de todos la demostración de la bastardez del informe su manipulación su sesgo y la mentira tanto hablar tanto pelear y debatir para que el tribunal vasco de cuentas públicas fiscalizara todo lo relativo a epsilon

solo se cite en el listado de documentación todo porque después de ocultar que el contrato lo redactó el asesor jurídico

por dos veces da por buena legal y correcta la operación en el parque tecnológico en dos mil nueve pues no le gustó al redactor y parece que nadie más pues nadie alega la citación de tal informe

porque puede pervertir la conclusión del informe le hurtamos tal verdad a la ciudadanía mientras se nos seguirá llenando la boca de transparencia

alguno va deslegitimando con una mano al propio tribunal vasco de cuentas y su politización mientras que con la otra tapan que el presidente de la comisión de investigación es quien ha trabajado directamente para echar un capote al propio presidente del tribunal vasco de cuentas

de intervención política sobre el tribunal absolutamente inimaginable y rechazable eso sí que es politización politización que deslegitima

el resto de la comisión sabrá por qué calla esto será que continúan en su ejercicio de transparencia aclárense si creen que el tribunal vasco de cuentas está politizado

politización torera por cierto si no lo está hagan uso de sus conclusiones les gusten o no

han votado que ni existen informes del tribunal vasco de cuentas ni correos electrónicos cruzados entre el presidente de la comisión y el presidente del tribunal vasco de cuentas viva la democracia de la ocultación

a nadie se le ocurre pensar que el cruce de correos entre el presidente de la comisión y el presidente del tribunal vasco de cuentas concluye en que este último

el único que cambia su criterio respecto a epsilon entre dos mil doce y dos mil catorce el señor churiaque aprobó la actuación del parque tecnológico del dos mil nueve

lo desaprobó no creo que solo el pnv se haya dado cuenta tengo para mí que el resto no quiere darse cuenta de que se ha dado cuenta por un lado todos ustedes se ponen de acuerdo en el absurdo de reprochar en las conclusiones y luego cargar en las responsabilidades al consejo vasco de promoción económica

en un ejercicio de cinismo político no le reprocha lo mismo a los gestores de los ministerios correspondientes de madrid

elegir entre cientos de proyectos y dar subvenciones a quien más puntos obtenía si fuesen transparentes sinceros políticos que juegan con la objetividad como frontispicio en ningún caso acusarían a nadie de tomar una decisión sobre un proyecto

calificaron como gran proyecto tecnológico y que luego por las razones que sea fracasó pero jamás fracasó porque el consejo vasco de promoción económica

cuántos proyectos aprobados por ese consejo y por otros tantos de aquí y de madrid y de bruselas y si me apuran de caracas

porque todos sabemos que estamos en un juego de mayorías de politiquilla de salón

ni qué decir del modo de actuar del redactor que en otro sutil giro semántico trapacero

y cito textual sic a las personas que formaban parte

tanto del consejo del parque como del consejo de promoción económica en el caso de hiriko y no pudiendo morder a nadie del pnv en aquella administración responsabiliza políticamente a la dirección de la spri no a las personas de la dirección de la spri parece que cuando gobernaba el pnv

lo hacía con entes abstractos para colmo eh bildu se suma al despropósito de desinformar y sugiere en sus alegaciones ciertas nominalizaciones

organismo que en ningún caso aparece como responsable en el caso e hiriko donde expresamente aparece se saltan varios escalones y recalan en un responsable técnico

puede ser responsable político de nada según bildu valoró malamente el proyecto y yo me pregunto y las otras decenas de proyectos que valoró positivamente y han triunfado también son responsabilidad política de él lo que pasa es que

para que contentando a quien representa los intereses políticos de aquel mandato de gobierno todos juntos en un ejercicio de hipocresía señalen a todo lo que huela a pnv

que saltarse el escalafón para señalar a un conserje porque un día estuvo

se dan cuenta del despropósito que todo esto significa del cinismo que representa retorcer los argumentos hasta lo imposible para intentar arrimar el ascua a su sardina aunque el ascua esté abrasada y la sardina absolutamente putrefacta no importa

y acumulan suficiente mayoría viva la honesta transparencia

pone de manifiesto la existencia de defectos e irregularidades

no les produce algo de desazón escucharlo y sobre todo suscribirlo

después de haber leído su texto he caído en las características abstrusas de su forma de ver ser y hacer política pero el resto se quedan tan tranquilos escuchando esta grosería que para nada responde objetivamente a la realidad este va a ser su ejercicio de sinceridad

reconoce que hay diversidad de opiniones jurídicas

porque parece que no han leído pero no por no querer leer por no querer enterarse porque leer

acarreará tarde o temprano problemas de conciencia que no las tenga el redactor

no les queden siquiera retazos y claro no pasa nada por decir como se dice en las conclusiones las subvenciones de la administración general del estado sic venían avaladas según declaró el secretario de estado de universidades e investigación

la pretensión del redactor del informe era de hacer pensar que se avalaban en sentido financiero del término

y explicó que el decreto obligaba a los parques a remitir los proyectos

pero en un sentido radicalmente diferente pero para qué explicarlo

claro que tampoco por ningún lado del informe encuentro decenas de frases emitidas por el mismo secretario de estado que dijo

yo diría que era un proyecto viable interesante y que por lo tanto merecía el apoyo de las administraciones públicas y también dijo sic y en cuanto

pueden ser proyectos empresariales pero son proyectos de investigación por parte de empresas y también dijo sic

garantizar la viabilidad de una empresa y también dijo sic si en aquella circunstancia yo me niego a firmar la propuesta que me hace

qué proyecto voy a apoyar lo dijo el secretario de estado y no lo pone nadie del informe

tomaron decisiones avaladas por juristas y el tribunal vasco de cuentas si tanta responsabilidad política tienen quienes basándose en informes técnicos calificaron de estratégico un proyecto

quienes desde sus cargos de madrid apoyaron los diferentes proyectos hoy aquí subjuzgados

y cuál la de los señores maroto y de andrés que con dineros públicos se fueron hasta bruselas para apoyar el mismo proyecto qué responsabilidad política tiene el anterior lehendakari y el anterior consejero de industria

el premio al mejor empresario del año dónde están las responsabilidades políticas de quienes desde cargos públicos apoyaron y animaron proyectos hoy fracasados

no hay responsabilidad políticas en aquellas actitudes de apoyo explicito al proyecto y sí la hay en un técnico de sprit que valoró el proyecto

que había que visitar proyectos estrellas dónde está aunque no fuimos partidarios de esta comisión

como así ha sido una vez constituida trabajamos para llegar a un acuerdo y concluir en una verdad lo más objetiva posible

para con los matices evidentes que cada personalidad y cada alma puede

pudiéramos llegar a una conclusión transparente que se pudiera presentar a los ciudadanos siempre estuvimos dispuestos a aceptar reproches siempre que estos fueran comprobables nuestras enmiendas son parciales precisamente con la pretensión de trabajar conjuntamente en la construcción de un relato entre todos a pesar del que he presentado

mentiroso y engañador con la ciudadanía y lo que es peor con la propia comisión que en su conciencia más profunda

una actuación de parlamentarios no dispuestos a hurgar en una verdad para terminar

a la que poner en juego para sus políticos intereses nada que se pueda parecer a la transparencia a la verdad y a la información sincera que a fin de cuentas es para lo que aquí

la verdad está ahí no es democrática no es votable y ustedes hoy votarán su verdad su interesada verdad nunca la verdad muchas gracias

gracias presidenta al menos el señor tellería ha afirmado que puede que se hayan hecho

políticamente en este parlamento y lo que denunciamos en la comisión que se han hecho muchas cosas mal y que responsables no son solamente unos sino bastantes

el partido nacionalista vasco el gobierno vasco por tomar determinadas decisiones y también el gobierno de españa nosotros este hecho no lo hemos negado y está incluido en las alegaciones cabe señalar antes que nada y recordar que el partido nacionalista vasco votó

de investigación entendemos nosotros porque no quería que se supiera la verdad de los hechos ocurridos y porque quería ocultar su mala gestión

por eso votó en contra de la creación de la comisión de investigación y por eso seguramente estuvo a punto de convencerle entre comillas al grupo socialista para que el grupo socialista

finalmente por causas que en principio no sabremos decidió abstenerse en todo caso el partido nacionalista vasco votó en contra de la creación de la comisión de investigación

han obstaculizado todo lo que pudieron los trabajos realizados en esa comisión todos los que hemos estado dentro lo hemos visto perfectamente ni un solo movimiento en positivo para saber la verdad de los hechos pero ahora resulta que el partido nacionalista vasco es la víctima el partido nacionalista vasco no es responsable de nada

todos hemos tratado de engañar a la ciudadanía el partido nacionalista no ha cometido ni un solo error parece ser que todo lo que está en ese dictamen es falso o tanta media verdad recoge que lo convierte en una falsedad entera ellos en boca de tellería han actuado perfectamente bien

no ha habido errores ni responsables ni culpables ni pérdida de dinero público no ha habido pérdida de dinero público como consecuencia de haber tomado una serie de decisiones perfectamente equivocadas no ha habido pérdida de dinero público no hay responsables en esta historia

en nuestra opinión sí y desde luego que compartimos todo lo que se recoge en ese dictamen en relación a las conclusiones a las recomendaciones y a las responsabilidades puede que el dictamen en fin sea

recoge la verdad de los hechos ocurridos no es

ni política contra nada ni contra nadie hemos buscado la verdad upyd ha tratado de buscar la verdad ha tratado de localizar a los responsables no hemos tratado de dañar a nuestros enemigos como decía el señor tellería

hemos querido señalar a los responsables políticos de dos proyectos teledirigidos fracasados y evidentemente las consecuencias que ha tenido este hecho millones de euros perdidos los ciudadanos este hecho me imagino que el señor tellería al menos no lo negará no han sido un verdadero fiasco estos dos proyectos nadie es responsable

quién es responsable de todo esto pues evidentemente hay responsables que están señalados ahí y evidentemente los que se señalan ahí y también el gobierno de españa tal como lo proponemos nosotros en nuestras alegaciones evidentemente el gobierno de españa también es responsable y escuchado al señor reyes nos reafirmamos en esta el gobierno de españa es responsable político de estos fiascos el gobierno vasco también pero el gobierno de españa también y esto hay que decirlo se acabó el mito

es un buen gestor mito defendido no solamente por el partido nacionalista vasco sino por otros partidos políticos acomplejados

gestionaba bien las cosas ese mito y esa gran mentira se acaba hoy el partido nacionalista vasco es

para beneficiar a los suyos la gestión del partido nacionalista vasco durante largos años ha consistido básicamente en esto todo

soterrada todo se reparte para que los amigos del partido nacionalista vasco obtengan beneficios esta es la realidad de los hechos y esto es el partido nacionalista vasco cuyas corruptelas están saliendo a la luz en los últimos tiempos sí cuyas corruptelas

en los últimos tiempos corruptelas de miembros del partido nacionalista vasco y en fin y esto evidencia que el partido nacionalista vasco no es un buen gestor

ya digo que es un buen gestor para los suyos para beneficiar a sus amigos señor reyes ustedes

esto de que nos negamos a bloquear la comisión de investigación ustedes no apoyaron la creación de la comisión de investigación señor reyes y finalmente se abstuvieron en última instancia porque quizá recapacitaron o

con el partido socialista de euskadi para votar en contra de la creación de la comisión de investigación pero

se abstuvieron no votaron a favor de ella

una actitud claramente boicoteadora que han corregido solamente en parte porque votarán a favor de este dictamen pero votarán en contra

mejoran claramente el dictamen y recuerdan también que el gobierno de españa es perfectamente responsable usted defiende esas negociaciones presupuestarias puestas en marcha entre el partido socialista y el partido nacionalista vasco y las considera legítimas serán legitimas

y algún día el partido socialista tendrá que pedir perdón por aceptar determinados en determinadas negociaciones presupuestarias negociaciones presupuestarias que lo mismo pueden valer para cambiar los nombres oficiales de las provincias vascas que para

de miembros destacados o amigos del partido nacionalista vasco si el gobierno vasco es responsable en este asunto el gobierno de españa también

dinero para el apoyo a estos proyectos señor reyes tiene que votar por lo tanto a favor de nuestras alegaciones tiene que votar

de este dictamen vote a favor de nuestras enmiendas para completarlo para que vaya más allá se cite expresamente a los nombres y a los apellidos responsables políticos de estos fiascos por qué votan en contra de que aparezcan los nombres y los apellidos señor reyes me lo puede explicar cuál es el pacto que ustedes han firmado impedir en última instancia que los nombres de determinados responsables que están aquí sin citarse puedan aparecer en el dictamen definitivo más cuando usted dijo en al comisión que básicamente era lo mismo porque aunque no aparecían los nombres

voten a favor de estas alegaciones para que aparezcan expresamente los nombres de esas personas y sepamos exactamente de quién estamos hablando

nos parece bien estamos de acuerdo con todo lo que se dice ahí hemos buscado siempre buscar la verdad hemos hecho el mejor trabajo posible que hemos podido

seguramente algunos sí otros no tanto y en todo caso nuestra voluntad no era dañar políticamente a nada ni a nadie sino conocer la verdad de los hechos ocurridos responsables políticos o gobiernos que toman decisiones equivocadas o irregulares o ilegales o precipitadas tienen que ser consciente de que tienen que responder por ellas y esto es lo que básicamente refleja

mejorable sí se podría mejorar por ejemplo se puede mejorar votando las enmiendas de upyd gracias eskerrik asko maneiro jauna

gracias presidenta yo me reafirmo en la idoneidad en la oportunidad

realizado con el dictamen ha sido un buen trabajo independientemente de

melodramática a una hiperbólica intervención claro

esa hipérbole esa exageración en relación con la búsqueda de la descalificación del dictamen es la única manera que ha encontrado el partido nacionalista vasco

la contundencia de los hechos no se esconda detrás de esas cuestiones

va a quedar en relación con lo que tiene que ser el trabajo de la cámara

del trabajo que se le va a obligar a hacer a instituciones al gobierno vasco en relación con abundar en la transparencia y en la eficacia de los procedimientos

hubiese sido una mejor actitud menos melodrama menos hipérbole

más entender que queda trabajo por hacer porque las cosas no se han hecho bien falacia medias verdades perversión de la verdad

argucias de la peor calaña trapacero es decir

sí que está inventando una realidad porque la verdad parlamentaria es la democracia la de la mayoría

la que a usted no le gusta pero la que está negro sobre blanco en un dictamen

medias verdades perversión de la verdad otros me dicen que soy suave que me falta contundencia que me he quedado corto que

moderado fíjese usted casi que estoy contento como estoy usted por un lado diciéndome esas todas esas cosas otros diciéndome que he sido moderado que he sido muy suave y que me he quedado corto

me parece que hemos acertado señor tellería

no va a ser usted quien me diga a mí con quién puedo o no puedo comunicarme además estamos hablando de transparencia

lo que hacen las instituciones los presidentes de las comisiones de investigación los presidentes del tribunal de cuentas el lehendakari y todo transparencia no va a ser usted quien me diga a mí con quién puedo o no puedo comunicarme permanentemente

reconocer que hay que tomar medidas y que eso no puede volver a producirse eso no lo ha dicho usted me gustaría habérselo oído pero no lo ha dicho y claro que sí

claro que rotundidad de los informes públicos y privados que ponían en entredicho la situación jurídica de las decisiones adoptadas en el parque y que la calificaban claro que sí y además avalados y ampliados y secundados por sentencias judiciales es que de eso estamos hablando

para ver las responsabilidades nosotros no podemos analizar las responsabilidades del gobierno central

las decisiones de dar dinero no podemos hacer una comisión de investigación ahí sí que hubiese sido extralimitación por nuestra parte el haber entrado en esa circunstancia nosotros por eso pedimos

analice fiscalice exhaustivamente la fiscalización de todas esas empresas

que en algunas ocasiones faltan datos y queremos ampliar esos datos por eso hacemos ese trabajo por eso hacemos esas instancias al tribunal de cuentas del reino tribunal de cuentas

eso es lo fundamental y claro que sí cómo que no vamos a valorar la actitud del señor unda pues claro que la valoramos

claro que ha sido un elemento importante a la hora de desentrañar la verdad claro que sí él y su equipo hicieron lo que tenían que hacer

es verdad y eso había que reconocerlo y lo ha dicho siempre además lo dijo antes y lo dijo cuando vino a la comisión de investigación y eso es el juego político y eso

importante del dictamen de la comisión de investigación porque importante fue la actitud que tuvo el anterior departamento de industria en relación con estas cuestiones que a usted le moleste es

el agujero en el que se tiene que meter para no ver la realidad en estas

efectivamente cómo no lo voy a reconocer y cómo no lo voy a ver si es verdad si gracias

desenmascarar determinados planteamientos y actitudes y es verdad lo décimos y lo ponemos negro sobre blanco consejo de promoción económica

la responsabilidad está ahí es inequívoca en relación con la falta de planes de negocio de viabilidad de empleos serios solventes y eso sí que lo hemos podido analizar y además se ha confirmado

lo referido al aval del parque tecnológico lo mismo y además que tanto

los estudios los análisis las decisiones del consejo de promoción económica como el propio aval del parque tecnológico en relación con estas cuestiones

de la aportación del gobierno central de esos dineros económicos aparte de la negociación presupuestaria

y en decisiones del consejo de promoción económica incorrectos o irregulares

bueno pues eso es así señor tellería ha sido

no solo del gobierno vasco ha sido un fracaso del pnv y está claro duele claro que tiene que doler

no son intocables ni son ustedes incuestionables

ni quienes hayan tomado estas decisiones ni quienes se hayan

intentos empresariales son seres humanos falibles y este mundo es de todos no solo del pnv y por eso estamos analizando cuestiones

pues la ponemos pero yo creo que el análisis que se ha hecho en el dictamen

como usted trata de hacer ver al revés yo creo que se fundamenta en lo positivo en el trabajo que tenemos por realizar yo creo que en ese sentido pues ahí están

lamento la falta de autocrítica ese atrincheramiento en el que se mueven a día de hoy yo creo que lo bueno

los trabajos de esta comisión de investigación no acaban hoy empiezan hoy si finalmente

va a haber trabajo va a haber deberes para el gobierno va a haber deberes para mejorar

que dictaminan proyectos empresariales yo creo que

y yo creo que hemos hecho un buen trabajo independientemente de que usted lo trate de ridiculizar o de descalificar y de arremeter contra él vuelvo a decir medias verdades

cortos vuelos pensamos que tanto lo que han sido las conclusiones

la identificación de las responsabilidades y las recomendaciones el trabajo está en un justo medio nosotros no podemos analizar

pero sí podemos instar a que se analicen y a que se investiguen por parte del tribunal de cuentas del reino lo vamos a hacer esperemos que sea recogido y sí que entendemos que el gobierno vasco tiene en este momento si el dictamen se aprueba

que tiene que hacer para mejorar para que los proyectos fracasados de epsilon e hiriko fundamentados en dinero público

ridículas irrisorias cantidades de dinero privado a lo que tenga que ser iniciativa empresarial iniciativa privada
no se vuelva a producir o si se produce seamos capaces de neutralizarlas antes de llegar a una comisión de investigación muchas gracias eskerrik asko

está claro que para algunos grupos políticos lo importante más que el objeto de la comisión es la rentabilidad política por eso al señor maneiro le voy a hacer solo un par de comentarios porque no voy a alimentar más su afán de protagonismo público que ha quedado demostrado

lo que principalmente le interesa dice ha dedicado más energía no sé si más tiempo pero más energía en sus dos intervenciones

que a profundizar en las conclusiones de la comisión de investigación pero está claro desde el principio que usted es uno de los que ha utilizado esta comisión en interés político

de la comisión que incluso un día que no asistió a la comisión hizo una nota de prensa y así todos los días lo cual a mí me parece

dice que no apoyamos la creación del comisión y como consta

en el pleno en que se decidió esto yo argumenté que

numerosas comparecencias de los que entendemos personas que podían aportar la mayor información la más ajustada

con fines de interés político para

que sino no tendría nos parecía que las comparecencias el trabajo en podía ser suficiente lo dije con claridad pero que en cualquier caso como todos queríamos saber la verdad y por eso no votamos a favor porque creíamos que no es la mejor fórmula pero nos abstuvimos con la absoluta

varias veces reclamando nuestro voto de que eso significaba que habría comisión de investigación luego imputar a esa abstención algún tipo de obstaculización

cuando no se puede en fin no quiero decir otro calificativo decía usted que o el exceso yo se lo veo aún más que si hemos firmado un pacto con el partido nacionalista vasco pues hombre

qué negocio habrá hecho el partido nacionalista vasco cuando hemos votado un dictamen

donde hay responsabilidades políticas de este señor o sea dónde es que es impresionante además atreverse a decir una cosa de estas que puede haber un pacto firmado cuando los hechos son los que son el partido socialista desde la pasada legislatura y anteriormente ha solicitado comparecencias desde un principio para aclarar este tema ha llevado a los tribunales el asunto es en un exceso con un interés

que el partido socialista no dejó de recibir la información en el transcurso de la comisión mire como muestra resulta que la representante del grupo socialista en la comisión en la mesa de la comisión le dio a usted amparo cuando reclamo que

se trajera a la comisión como usted solicitaba y eso es un hecho lo que ocurre es que usted sale aquí a veces con

disparando contra todo lo que se mueve diciendo cualquier cosa e incitando a los demás la película que a usted le hubiera gustado protagonizar

pero cómo es posible que cuando se ha asignado a cada uno comparecencias que ha agotado todas las que ha querido cómo es posible

lo que pretenden es dilatar el trabajo de un comisión en la que hay carne política para

permanentemente con excesos impunes políticamente con excesos verbales impunes políticamente y eso es

socialista con el dictamen que llega a este pleno pero no la exhibición pública de excesos verbales

irresponsables en el fondo en el fondo y en la superficie porque lo dijo usted

haya votado a favor y votará hoy también el dictamen de la comisión lo dijo expresamente y consta en el acta de la comisión cuando presentó sus tres alegaciones el grupo socialista dijo usted textualmente en la comisión que no las votaba porque votábamos el dictamen aun

al menos con las dos primeras y la primera hablaba precisamente del asunto de las patentes para que el gobierno actuara que era lo que usted también deseaba y que luego hizo

sino que verbalizó dijo expresamente porque votábamos el dictamen es decir usted no nos considera

o más bien le molesta que lo votemos porque no ayuda

es un hecho eso no es un exceso retórico le emplazo a que diga que es mentira y que veamos

eso es así lo cual indica cómo actúa bildu políticamente

señor telleria yo creo que su actuación

dictamen para no entrar en el fondo de la cuestión y tapar las vergüenzas de aquellos que se apuntan como responsables

pero que deja mucho que desear respecto a la autocrítica mínima al menos

uno espera de un partido como el partido nacionalista vasco por eso me parece que su actuación ha ido

más allá de lo que corresponde una buena defensa parlamentaria

en mi opinión dice usted que además del ponente el señor barrio al resto de los grupos nos tienen que quedar problemas

y yo lo que le digo es que

y al acusar o comparar al gobierno socialista pasado

que lo ha hecho y tengo que contestarle porque resulta

aparte de lo que le parezca a usted de apreciación respecto al contenido literal del acuerdo lo que está no puede dejar de estar incluido

no puede dejar de estar porque lo que destila el conjunto de las actuaciones que hemos visto es que

la convivencia de personas que venían a la ubre de la administración pública a nutrirse para proyectos que no tenían capital privado

en el caso de miñano de la cesión del rango hipotecario se hizo algo que no solo no es habitual sino que tenía apariencia de ilegalidad y que como dice

había quedarle una vuelta

aceptable por eso es tan importante que esté porque es la intención de cómo se hizo el asunto lo que refleja

y entonces no es lo mismo la actuación de un gobierno socialista ni de un grupo el socialista que solicitó comparecencias desde el principio de los responsables políticos de los departamentos de la consejera de industria para conocer los hechos para y llevó cuando llegó al gobierno a la fiscalía un informe de lo que se encontró

en vías de solución de los asuntos de conocer lo que ocurrió y de disminuir el daño no es lo mismo eso que un gobierno

y que uno que ahora no hace al menos alguna autocrítica de lo sucedido eskerrik asko reyes jauna